gracias señora presidenta buenos días a los afectados los representantes de los afectados por el amianto en esta cámara
desde el grupo popular hemos votado a favor de este informe teniendo claro

de mínimos desde el grupo popular estamos totalmente de acuerdo y coincidimos en la necesidad de crear un fondo de compensación para resarcir a las víctimas

demostrar vínculo con una empresa concreta tal y como se ha detallado en el informe la ponencia se inicia por acuerdo de esta cámara de constituir una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido fines y responsabilidades de un posible fondo de compensación del amianto dentro del contexto europeo que elevará sus conclusiones en términos de propuestas con el fin de que sus recomendaciones puedan incorporarse a la estrategia vasca de salud laboral el informe recoge todos los factores que pueden ser determinantes a la hora de la creación del fondo

por el gran capital de conocimiento sobre el amianto los efectos y las graves secuelas que ha provocado en miles de personas hay un dato señorías que no se recoge en el informe pero que para el grupo popular es muy importante

de la seguridad social el número de partes de comunicados por grupo de enfermedad a gente causante y comunidad autónoma

que la tasa de cáncer por enfermedad profesional y que fundamentalmente es el amianto dentro de los cancerígenos en el país vasco es de tres coma veintiocho

nos debe hacer reflexionar es un dato lo suficientemente alarmante y que desde luego para el grupo popular nos lleva a pensar que paralelo a la posible creación de un fondo es necesario abordar otros aspectos que también aliviarían la situación que padecen los afectados y que también han sido expuestos en la ponencia por algunos ponentes me refiero a actuaciones que desde el gobierno vasco se deben de poner en marcha ya

ofreció a la asociación de afectados por el amianto la elaboración de un plan de amianto un plan que entendemos desde el grupo popular debe establecer medidas para reparar
a los afectados y sus familias los daños causados por el amianto mesedez isiltasuna desde el gobierno vasco

y desde distintos departamentos poner más alerta sobre el amianto y los

en las actuaciones de los departamentos principalmente vivienda salud trabajo y medio ambiente y son varias las actuaciones que desde cada departamento se puede hacer desde la consejería de trabajo se puede y se debe actualizar el rera el registro de empresas

hoy solo están registradas las empresas que se ocupan de los protocolos de desamiantado osalan ya advirtió en la ponencia que se ha encontrado amianto y exposición a amianto en muchísimas empresas que no están registradas señorías esto

porque la aplicación de los protocolos va a depender y depende en gran medida de ese registro por lo tanto si queremos que las aplicaciones sean

acertadas posibles hay que tener mayor rigor en los listados de trabajadores que han podido estar expuestos

reforzar campañas de información sobre problemática del amianto en grupos que potencialmente han podido estar expuestos desde la consejería de sanidad mayor coordinación con osalan para aplicación de los protocolos de vigilancia sanitaria específica creación de unidades específicas

protocolos ante nuevos casos afectados de amianto desde el departamento de vivienda control de licencias de obras de rehabilitación en edificios coordinación con osalan

reiteradas veces en la ponencia falta coordinación coordinación entre los departamentos

en modo de enmiendas a los presupuestos del dos mil quince presentamos en esta cámara con el objeto de ayudar a los afectados o familiares para que puedan hacer frente a los gastos que deben afrontar en pruebas médicas

desde el grupo popular entendemos que nos queda un trabajo importante para que por ejemplo la estrategia vasca de salud laboral tenga un apartado específico sobre el amianto

de elaborar un plan de amianto amaitu mesedez estamos satisfechos por el acuerdo alcanzado

de mínimos nos queda mucho trabajo en esta cámara por hacer eskerrik asko lópez de ocariz andrea alderdi sozialistaren ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

a través del tiempo mucho tiempo esta legislatura y la anterior ha ocupado la ponencia de amianto por lo tanto

pero decir que en todo caso estamos aquí precisamente para auspiciar para impulsar

y voy a explicar en este momento por qué hemos votado nosotros a favor de este informe españa ingresó en la organización internacional del trabajo en mil novecientos diecinueve y salvo el periodo mil novecientos cuarenta y uno mil novecientos cincuenta y seis que estuvo ausente ha suscrito los convenios y las recomendaciones que emanan de esas conferencias que lleva a cabo la organización internacional del trabajo en cuyo artículo diecinueve de la constitución de dicho organismo

en el caso de las recomendaciones se comunicarán a todos los miembros para su examen a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo

existe una recomendación sobre el asbesto que es hablar del amianto de mil novecientos ochenta y seis que en el apartado treinta y cinco dice la legislación nacional ser refiere a los estados miembros de esa

de conformidad con el convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales convenio de mil novecientos sesenta y cuatro por otra parte existe un memorándum de esta misma organización

y dice la autoridad competente es aquella que tenga de acuerdo con la constitución nacional de cada estado el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones la autoridad competente debe ser normalmente el legislativo las disposiciones del artículo diecinueve de la constitución de la oit

los instrumentos adoptados por la conferencia sin excepción y sin distinción alguna entre los convenios y las recomendaciones en virtud disposiciones formales del artículo diecinueve de la constitución la sumisión de los textos adoptados

esto quiere decir que hay una habilitación en los tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho interno

los daños que sufren las personas afectadas por el amianto esa es la razón por la que nosotros hemos votado a favor de ese informe pero entendemos como decía la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra de que estamos a medio camino este

y por lo tanto su trabajo no debe acabar aquí sino que debe de continuar llevando adelante esa iniciativa a donde corresponde además de todo lo dicho

responsabilidad genérica una responsabilidad patrimonial por daños ambientales porque todos estos productos se importaron se comercializaron se distribuyeron y efectivamente hubo normas normas de seguridad laboral que trataban de proteger contra los riesgos pero es evidente que no fueron suficientes

acaecidos demuestran que los medios puestos no fueron suficientes para proteger a los trabajadores de esa exposición y esta es la razón por la que nosotros hemos votado a favor del informe y esta es la razón por la que seguimos insistiendo que el trabajo no acaba aquí sino que debemos emprender una tarea común y compartida tal y como hemos

consensuado en este informe para llevar esta iniciativa legislativa al congreso de los diputados nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

izan dira eta izaten ari dira y lo cierto es que no solo pierden los trabajadores por haber tenido contacto con el amianto sin saber a lo que se estaban exponiendo

a día de hoy están afectados por este mineral llevan años sufriéndolo

a nuestro entender desahuciados por las instituciones luchando y litigando en absoluta soledad para que su dolencia se reconozca como enfermedad profesional

creemos que es momento de que se den pasos por testimoniales que sean para sacar a este colectivo de la sombra y por eso nuestro voto favorable al dictamen de la ponencia

por unanimidad pero también queremos anunciar que este paso no es más que el inicio

quedan muchos aspectos por resolver como la creación del mapa del amianto

estamos ante un problema que no ha desaparecido ya que la exposición de fibras de amianto está presente

y en la actualidad los trabajadores y trabajadoras siguen corriendo un riesgo elevado por realizar

además este mineral tóxico también provoca muertes por su inhalación más allá del mundo laboral y eso tampoco podemos olvidarlo beraz

egun on denoi el dictamen marca el camino el largo camino a seguir al que algunos

marca la respuesta institucional necesaria para enfrentarnos a un cambio en la realidad un cambio en la realidad que ha generado y desgraciadamente seguirá generando en los próximos años situaciones injustas afectados víctimas inocentes aurreko mendeko hirurogei

zitzakeen kalteak bere toxititatea el riesgo de su toxicidad

el amianto de tal forma que puede desprenderse al ambiente sus fibras pueden ser inhaladas y depositarse dentro del organismo el organismo es incapaz de eliminar esa fibra y se da una evolución durante el periodo de latencia hacia la enfermedad

mesotelioma que deriva necesariamente de una exposición al amianto por lo que hay que buscar esa exposición en la vida laboral de la persona afectada o como otras como el cáncer de pulmón también puede producir lesiones no mortales pero severas

en el estado está prohibida su utilización como ya se ha comentado desde dos mil uno y la única actividad permitida que genera una exposición es la retirada del amianto ya colocado con anterioridad a esa fecha realizada por empresas específicamente autorizadas y registradas

a pesar de la prohibición puede seguir dañando a la salud al existir aún gran cantidad de material que lo contiene el número de afectados es realmente elevado según los registros de mortalidad en el estado entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil ocho fallecieron de mesotelioma

y como también se ha comentado anteriormente la estimación nos dice que seguirán aumentando hasta los años dos mil veinte dos mil veinticinco además nos encontramos con una problemática para la compensación de las patologías

es muy prolongado sin duda como decía un cambio en la realidad en un periodo de tiempo muy corto hemos pasado de

enfrentarnos a una realidad de producto milagro utilizado masivamente

enfermas o en estado de latencia un cambio en la realidad

sus familias las personas en estado latente toda la sociedad en definitiva que necesita de respuesta desde las instituciones la prohibición en la producción

así como el seguimiento y la atención sanitaria a los afectados y la investigación de la enfermedad aun siendo medidas esencialmente necesarias y a valorar positivamente tengamos en cuenta que aún hay países como cuba china rusia bastantes países del tercer mundo donde no está prohibido el amianto y se sigue fabricando y usando

no son suficientes para una sociedad que quiera considerarse solidaria y avanzada en este escenario nace esta ponencia en la pasada legislatura

como objeto analizar la posible creación de un fondo de compensación para los afectados por la exposición al amianto el estudio y el análisis de su idoneidad y los beneficios de su creación

una respuesta desde este parlamento a esta nueva realidad donde hay que reconocer

las aportaciones de los comparecientes los afectados sus familias la visión de los sindicatos de las empresas de los profesionales sanitarios de los investigadores de los profesionales jurídicos de la administración vasca materializada en las importantes aportaciones desde osalan

que de una forma pionera en el estadohan decidido afrontar uno de los temas más graves a los que se enfrentan miles de trabajadores familiares de trabajadores y ciudadanos

es por ello que apoyamos firmemente lo que este dictamen recoge

argibide edo soluzio bat lortzeko gai garen el problema al que nos enfrentamos no es

estamos hablando de una infección que se cronifica en un setenta por ciento de los pacientes y que produce cirrosis en un veinte por ciento de esos pacientes

de cirrosis de carcinoma hepático y por tanto también de trasplante pero lo cierto es que actualmente existen unos tratamientos tan eficaces como para curar esta infección que inhibe la replicación viral definitivamente y lo hacen además

y que seguro que a ustedes también les consta se soluciona o se alivia con información pero la falta de información o lo que es peor desespera por eso nuestra moción la propuesta que eh bildu ha traído a esta cámara y que ha desembocado en una enmienda transaccional que creemos que es buena y que contribuirá tanto a tranquilizar a estos enfermos y enfermas como a clarificar ciertos aspectos

ez du ukatu todo esto y mucho más es lo que pretendemos aclarar porque nuestro único fin lo hemos repetido hasta la saciedad es mejorar la situación y la calidad de vida de estos enfermos y enfermas queremos que quede claro y por escrito que el gobierno vasco garantice el tratamiento con los nuevos antivirales

según los criterios clínicos que están aprobados independientemente del coste económico que ello suponga ese es el primer punto de nuestra enmienda transaccional

y si no es por un motivo económico no se nos ocurre por que otra cuestión puede ser consideramos prioritario que el gobierno nada más comenzar el siguiente periodo de sesiones presente en este parlamento un cronograma detallado donde se explique con claridad

y eso es lo que solicitamos en el segundo punto de nuestro acuerdo asmo onenekin

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburu jauna los socialistas participamos en este debate

en particular el colectivo de enfermos

quieren ser tratados con fármacos curativos evitando que su enfermedad progrese

que su hígado fracase finalmente que desemboquen un cáncer que necesite un transplante o que el paciente fallezca

de su hígado y como le responde el departamento de salud

insolidaria e insuficientemente dice que no puede o que no procede tratar a todos

pero no terminará con ellos antes de enero del dieciséis y que los grados de afectación menores los f tres

que ya pueden esperar a ver que su proceso sea agravado para que puedan ser tratados y en este parlamento hemos tenido conocimiento de que los enfermos de hepatitis cien han tenido que organizarse como plataforma

para participar y conocer los planteamientos del gobierno con ellos no obstante a la raíz de una paralización tanto del diálogo con el colectivo como la paralización en los tratamiento curativos

manifestaciones que no le han gustado al departamento porque tienen nula

pero en el parlamento no coincidimos con esta visión de la realidad que tiene claro los grupos de la oposición no el grupo que sustenta al gobierno

hemos manifestado nuestra oposición a la política del gobierno y con la aportación a la moción queremos manifestar nuestra voluntad política que es que el gobierno trate con fármacos curativos de reciente aparición

priorizando la atención en el tiempo naturalmente a los más graves para evitar males mayores como es la evolución hacia el cáncer la necesidad de un trasplante o

para evitar el progreso de la enfermedad que hay que tratar a todos los pacientes

es también la opinión técnica del director del señor joan rodés teixidor presidente del plan estratégico nacional

en el sistema nacional de salud quien ya en marzo del dos mil quince en una entrevista

manifestaba que y esto me parece clarificador y muy importante a la hora de abordar la oferta de tratamientos al colectivo de hepatitis

antes de que aparezca la cirrosis porque si ya la hay con el tratamiento lo único que hacemos es quitar el virus pero la cirrosis permanece

decía también que el papel del ministerio sería la negociación con las farmacéuticas para conseguir

pero la financiación concreta es responsabilidad autonómica de esta y de las otras autonomías y los médicos prescriben pero no financian no pueden aportar la financiación esa es responsabilidad del departamento quien debe dar los recursos suficientes económicos a cada gerente de hospital para que dé a su vez el tratamiento a los pacientes

reciben los tratamientos a través de los hospitales continúa el señor rodés que me parece

opiniones técnicas que puedan con rigor diferenciarse de este la f esa clasificación de los pacientes de hepatitis cien quiere decir fibrosis

significa que hay enfermedad pero que no hay fibrosis

f dos f tres y f cuatro quiere decir que además de enfermedad hay fibrosis

de cirrosis de cáncer y de necesidad de trasplante

y hay pacientes mucho más graves que está claro a los que se debe abordar el tratamiento pero que se sepa que dar el tratamiento a la f cuatro

va a eliminar el virus pero no va a curar la cirrosis y ese paciente puede que evoluciones a necesidad de trasplante o a cáncer

es también obligatorio como se hace con el resto de las enfermedades infecciosas y también en otras no infecciosas

no esperamos a que los procesos evolucionen para ofrecerles el tratamiento y es que no solo es lo que procede por obligación de los poderes públicos con el ciudadano sino también por obligación de gestionar los recursos públicos con eficacia

y a nadie se le escapa que es más eficiente recuperar a un paciente curado que se pueda reintegrar a su trabajo y a su vida plena

que no pueda trabajar con los costes vitales sociales bajas laborales el tratamiento con medicamentos no curativos que también cuestan dinero posibles ingresos hospitalarios trasplantes tratamientos oncológicos en el caso de que aparezca el cáncer

supone continuar gastando dinero del erario público todo esto es lo que nos ha motivado a participar mediante una enmienda y una transacción con el grupo eh bildu

de tratamiento a todos los pacientes a la vez que denunciamos la actitud insolidaria e insuficiente del departamento de salud y que quede claro que existe un incumplimiento de sus obligaciones como es encontrar la financiación suficiente y necesaria para tratar a este colectivo con equidad con equidad con el resto

eso es lo que pide el colectivo y nosotros también apoyamos eskerrik asko roncal andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

si entre todos los grupos parlamentarios incluido el grupo que apoya al gobierno conseguimos unir fuerzas para

de esta cámara y también compartido por el propio gobierno vasco y por el propio señor darpón aquí presente por un lado que todos los enfermos de hepatitis cien reciban el tratamiento que necesitan

sin que su coste sea impedimento para recibirlo y por otro lado que estos mismos enfermos se sientan perfectamente atendidos y bien tratados e informados

y no entenderíamos que el grupo nacionalistas vascos no defendiera esto mismo y por lo tanto no se sumara a esa transaccional que ha sido firmada digo esto porque

a todos los pacientes mientras que los pacientes han venido criticando permanentemente y muy contundentemente la falta de atención y de sensibilidad del gobierno vasco en todo caso lo que pretendemos es que todo esto se solucione

no pueda hacerlo únicamente basta con tener voluntad política y un mínimo de sensibilidad upyd se ha venido uniendo a las reivindicaciones de las distintas asociaciones y afectados por el virus de la hepatitis cien ha participado en las movilizaciones que se registraron también en madrid además presentamos una batería de preguntas en el congreso de los diputados sobre la cuestión y en el parlamento europeo

nuestras sus reivindicaciones en euskadi compartimos hace aproximadamente mes y medio rueda de prensa con las plataformas vascas de afectados una rueda de prensa en la que los afectados dijeron cosas muy contundentes y que efectivamente al señor darpón pues no le gustaron del todo

y de suministrar los nuevos fármacos exclusivamente en los casos más graves dijeron sentirse maltratados engañados y abandonados

de genocidio pero lo cierto es que dijeron que se sentían y se sienten maltratados engañados y abandonados y alguna responsabilidad tendrá obviamente de esto el gobierno vasco y el departamento de salud

gravedad catalogados como f cuatro hasta enero de dos mil dieciséis otras comunidades autónomas les están dando también a los f dos y f tres no solo no somos los primeros ni los mejores como dicen dijeron

pasas el resto a esperar o a emigrar a burgos o a la rioja afirmaron nos tratan en el mejor de los casos como personas ingenuas y en el peor vienen a acusarnos de egoístas que queremos poner en peligro el sistema sanitario

el tratamiento en otras comunidades autónomas el plan se está cumpliendo no queremos ser más que los demás pero tampoco menos todas estas cosas y algunas otras dijeron los afectados en aquella rueda de prensa que tan poco gustó al gobierno vasco

los fármacos de última generación en función de su gravedad así mismo aseguró que todos los pacientes afectados van a ser tratados de forma progresiva

la cuestión todos pidieron y pedimos al consejero una misma cosa dividida en dos que se atienda a los enfermos de hepatitis cien siguiendo criterios clínicos el coste del tratamiento no sea un impedimento para ello me gustaría escuchar al representante del partido nacionalista vasco que está de acuerdo con estos objetivos compartidos el señor darpón defendió la forma de actuar de su departamento como no podía ser de otra manera pero en demasiadas ocasiones en la sostenibilidad del sistema sanitario público dando una sensación e imagen de estar con un ojo en el tratamiento médico y con otro en el presupuesto dicho de otro modo parecía que el presupuesto condicionaba el tratamiento médico dispensado por lo tanto

en aquellos debates no solamente no ha aclarado gran cosa sino que muchas dudas llegados a este punto en fin necesitamos claridad y compromisos esto es lo que básicamente pedimos al departamento de salud

compromiso por parte del gobierno vasco de que atenderá como merecen a cada uno de los enfermos vascos y que no escatimará para ello recursos presupuestarios y obviamente un programa de financiación tal como ayer mismo se lo reclamaba la plataforma de hepatitis cien

y porque en todo caso hay que atender a los pacientes como merecen sin escatimar medios de ningún tipo para ello

los mejores medicamentos sea como fuere esperamos que el asunto

estén a la altura de las circunstancias nosotros confiamos en que esto pueda ser así hay veces que determinados representantes políticos se mantienen en su propia burbuja y prefieren mantenerse en su más absoluta soledad antes de escuchar los planteamientos razonables

además me está dando la razón quiere mantenerse en su propia burbuja enhorabuena señor darpón por decir que sí que quiere mantenerse en su propia burbuja

yo creo que sería un buen paso que todos hoy votemos a favor de esta transaccional y que el gobierno vasco cumpla lo que se le reclama me parece que es bastante razonable lo que aparece en esa transaccional lo lógico es que

a los enfermos más leves de tal forma que no empeoren aunque en principio sea caro en el fondo representará un gran beneficio para los enfermos y también supondrá un ahorro

miles de pruebas diagnósticas decenas de ingresos tratamientos de otros tipos

y a la seguridad social también miles de días de bajas laborales por lo tanto lo razonable creo que es defender y no solamente votar lo que se propone en esa transaccional instar al gobierno por lo tanto a que garantice el tratamiento con los nuevos antivirales

siguiendo los criterios clínicos aprobados y sin reparar

establecer y presentar ante la cámara un cronograma detallado para establecer

y presentar un informe detallado de presupuesto destinado a la cobertura de los

finalmente evidentemente solidarizarnos con todas las personas afectadas por

unirnos a las reivindicaciones de las asociaciones que lo representan e instar al gobierno a que impulse su participación de tal forma

atendidos e informados y de esa forma no se sigan sintiendo como se han sentido hasta ahora abandonados por parte de este gobierno creo que en esa transaccional muy completas se incluyen también todo lo que desde upyd proponíamos con nuestra enmienda

favorable de todos los grupos de esta cámara sin excepción también el voto favorable del grupo nacionalistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna

no entendemos qué está pasando el gobierno vasco podemos decir que está desatendiendo sus responsabilidades

se está negando el tratamiento incluso a los pacientes clasificados como más graves f cuatro

enfermos también a los que en principio se les prescribe el tratamiento según los especialistas de acuerdo obviamente a criterios clínicos y

para dar esos nuevos tratamientos esto señor consejero es lo que está pasando y usted obviamente lo debería conocer o más bien yo creo que lo conoce

hemos conocido también incluso que a raíz de determinadas reivindicaciones incluso presiones concretas

nos resulta muy preocupante muy llamativo porque denota que puede incluso haber un cierto margen de discrecionalidad a la hora de dar

plasmó en la comparecencia por parte de los afectados y los representantes de la

nosotros desde el partido popular desde el grupo popular solicitamos que se den los tratamientos a todas aquellas personas que lo necesiten y se les prescriban de acuerdo a criterios

f cuatro que sabemos y tenemos constancia que algunos no se les está dando como se lo dije consejero en mi pregunta y que se les está diciendo vuelva usted mañana

que obviamente sí pueden de acuerdo a esa prescripción recibir estos tratamientos esos nuevos antivirales y que permitirían además que no se agrave su enfermedad como se ha dicho también en esta tribuna

y en ese sentido creemos que el consejero y el departamento no está cumpliendo sus propios compromisos que no se están siguiendo los criterios del plan estratégico para

esos criterios que fueron aprobados en un consejo interterritorial por unanimidad donde estaban todas las comunidades autónomas

y parece que donde dijo que sí luego está diciendo que no

el gobierno vasco el departamento que usted dirige el gobierno vasco este gobierno no está cumpliendo esos compromisos a los que se ha comprometido o ha adquirido en relación a esta estrategia

implantarla aquí hay un plan específico ha habido distintos planes

la comunidad autónoma vasca la ultima de once de mayo pero es que parece ser que ustedes tampoco están dando cumplimiento a sus propias previsiones por otra parte hemos dicho que el gobierno vasco está ocultando información en relación a los casos de hepatitis cien y en relación no solo a los casos

en relación a los recursos necesarios o los recursos económicos que serían necesarios para dar a todos los pacientes que requerirían estos tratamientos es más se nos da incluso información ambigua información no precisa porque se nos dice desde junio

con un coste de veinte millónes pero no se nos dice a preguntas reiteradas que hemos hecho este grupo y otros representantes en esta cámara de mayo hasta ahora cuántos se ha atendido por qué no se están cumpliendo aspectos de la estrategia

cuánto dinero hace falta exactamente para cubrir los tratamientos porque luego por otra parte el consejero en sus reiteradas comparecencias está diciendo que no es un problema económico

por qué no se amplía la partida presupuestaria si no es un problema económico dónde está el problema porque no entendemos nadie en esta cámara y los afectados indudablemente dónde puede estar el problema yo creo que al final falta voluntad política para abordar y resolver la problemática de los enfermos de hepatitis cien en euskadi señorías estamos hablando de una enfermedad crónica progresiva por lo tanto estas personas cuanto antes reciban el tratamiento mejor y antes se podrán curar y antes podrán también tener una mejor calidad de vida y por otra parte también nos parece

debatido sobre esta cuestión en esta cámara o cada vez que el consejero ha respondido a las preguntas que hemos formulado los distintos grupos de la oposición

aquí todos tienen la culpa menos el señor consejero que si el ministerio que si no pero si ustedes dieron el plácet a una

interterritorial y lo que está pasando es que los pacientes en euskadi están siendo discriminados y perjudicados respecto a los pacientes de otras comunidades autónomas que sí están llevando a cabo

la sensación que con esa priorización o esa atención de forma escalonada a los enfermos se está buscando vía de escape y una excusa para no dar la atención a los enfermos que de acuerdo a los criterios clínicos lo pueden precisar por eso nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción aunque prácticamente coincidíamos

se plasmaban pero nos parece importante recordar a este gobierno que tiene que garantizar los nuevos tratamientos a todos los enfermos de hepatitis cien de acuerdo a esos criterios clínicos y de acuerdo a los criterios

del sistema nacional de salud aprobado en el consejo interterritorial

con los nuevos tratamientos a los enfermos de hepatitis cien que obviamente se presente un informe en relación

nos parece oportuna la transacción a la que se ha llegado y en la que se ponen deberes concretos al gobierno vasco y en la que ya

que este consejero este gobierno asuma su responsabilidad y dé la respuesta que requieren estos

a la atención a los nuevos tratamientos besterik gabe eskerrik asko eta horrexegatik gure

egun on denoi berriro antes de nada desde nuestro grupo parlamentario queremos trasladar nuestra más profunda

han sido muchas las enfermedades que a base de tesón y avance de la ciencia han sido derrotadas por las personas

en la lucha por el derecho a la salud que han marcado páginas de la historia y hoy en estas últimas fechas y aunque pueda parecer lo contrario al escuchar las intervenciones que me han precedido

las personas de ciencia en este campo las y los hepatólogos y otros investigadores nos dicen que esta enfermedad tan grave tiene un nuevo tratamiento sustancialmente más eficaz nos anuncian en los últimos congresos de la especialidad que esta infección por virus con una fijación clara por el hígado y con una evolución muy variable y que hasta ahora se había tratado con fármacos que chocaban con la alta mutabilidad del virus y con tratamientos

ha llegado a un punto de inflexión los nuevos tratamientos permitirán erradicar la enfermedad en un plazo de aproximadamente quince años erradicar una enfermedad en un futuro cercano una noticia realmente buena y hoy debatimos en esta cámara una moción consecuencia de interpelación sobre esta cuestión

hace un par de semanas hubiesemos debatido una proposición no de ley sobre esta misma cuestión que a última hora retiró el grupo proponente

y si me centro en un análisis sereno de la iniciativa original

aquella proposición no de ley y de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios concluiría que se planteaba un debate serio definición de protocolos estrategias terapéuticas participación de los profesionales

aspectos epidemiológicos asistenciales y preventivos abordaje completo de la enfermedad en principio los mejores ingredientes para avanzar

sin embargo ustedes tres señora garrido señora blanco y señora roncal han convertido este debate en un sainete que sería cómico

y el de sus familias ni este grupo parlamentario ni el gobierno vasco

y menos a las personas enfermas ustedes han teatralizado este debate

ustedes con su presencia en la rueda de prensa del jueves quince de mayo en plena campaña electoral

ustedes continuaron con su trágico sainete el viernes veintinueve de mayo en el pleno de control formulando al consejero preguntas vacías sí vacías preguntas que competían entre ellas mismas en falta de rigor y sobreactuación

he diseccionado al detalle cada una de sus preguntas ni un solo dato absoluta falta de rigor después llegó el capítulo de la retirada de la proposición no de ley

la interpelación del doce de junio y por fin esta moción consecuencia de la misma y hoy me pregunto por qué una buena noticia

la respuesta es clara por su desorbitado apetito de utilización política sin la más mínima sensibilidad sin límite alguno

ni personas que sufren ni personas enfermas que sufren

hemos podido observar en las últimas fechas el actuar del departamento y en concreto en los dos últimos plenos de control las respuestas del consejero

y de respuestas insuficientes realmente yo lo que he visto es esperanza sensibilidad rigor y compromiso

una buena noticia una enfermedad grave la hepatitis cien dispone de un nuevo tratamiento más eficaz que va a beneficiar a las personas enfermas sensibilidad

alejando el debate de la utilización política diciendo alto y claro como nos dice el consejero

se va a seguir abordando esta enfermedad como un problema de salud rigor rigor en los hechos no improvisación

osakidetza incorporaba la atención de los pacientes en noviembre el ministerio autorizaba sofosbuvir que se empezó a utilizar en osakidetza en diciembre

se aprobaron para su uso en el estado el once de mayo los profesionales de osakidetza tenían a su disposición para uso en sus pacientes ello nos da una idea clara de la celeridad y la normalidad

de una forma ordenada y eficiente y siempre anteponiendo criterios médicos rigor rigor pacientes tratados

escalonadamente señora roncal sí priorizando como nos recuerda el doctor garcía bengoechea eminente patólogo y le cito siempre hemos priorizado porque la evolución es muy variable hace veinte años teníamos que hacer una biopsia pero hoy tenemos un aparato de fibroscan que nos da una aproximación muy buena del grado de fibrosis

algo mejor les decíamos a los pacientes y afortunadamente ese día ha llegado pero hay que seguir priorizando

en un margen de pocos meses no solo es un problema económico es que los servicios asistenciales no están capacitados no hay tantos hepatólogos para controlar eso también podemos hablar del planteamiento de la priorización que se recoge en el plan estratégico

al doctor rodés en la línea estratégica dos del plan página cincuenta y ocho como ya se ha dicho en la estrategia de priorización

y fíjense en las flechitas del cronograma también muy ilustrativas vamos lo que osakidetza está haciendo se han tratado ya en euskadi

muy por encima de los datos que proporciona cualquier otra comunidad autónoma y muy por encima de lo recogido en la estratégia solo hay que acudir a su anexo cuatro página ochenta y ocho y siguientes

con una calculadora al lado nada más que eso saquen las cuentas

muy por encima señora garrido muy por encima del plan estratégico saque las cuentas cada día que ustedes mantienen este sainete

rigor rigor en el gasto inversión en salud pagando los tratamientos dispensados a través del presupuesto del gobierno vasco veinte millónes de euros

por la sostenibilidad del sistema sanitario público algo que parece que ha dejado de ser normal en otras comunidades autónomas revisen las fórmulas financieras del anexo cuatro revísenlas un plan estratégico sin memoria económica konpromisoa osakidetzak

eta hala izango da pero por eso mantenemos desde este grupo parlamentario la misma posición que mantuvimos en la proposición

de nuestra postura los datos y los hechos están ahí y son la prueba son el aval más claro de lo que este gobierno vasco está haciendo

agradecer primero la disposición del grupo socialista por firmar esta enmienda transaccional con eh bildu y agradecer también el apoyo tanto de upyd como del partido popular

a qué ha venido usted a cuestionar mi trabajo como parlamentaria a eso ha venido se cree usted con licencia para hacerlo a vuelto a sacar el tema de la pnl oiga ese argumento ya lo utilizó el consejero hace dos semanas

esa pnl estaba registrada en enero la situación ha cambiado

estamos en nuestro derecho creo pero es que usted ha hablado de todo menos del contenido de la moción qué le parece

punto por punto el acuerdo transaccional que hemos firmado no se ha posicionado

va a votar en contra de que se garantice el tratamiento

no están de acuerdo tampoco con que se presente en esta cámara un cronograma donde se

no está de acuerdo en que se presente en esta cámara el presupuesto detallado antes de la presentación del presupuesto dos mil dieciséis lo que sí parece es que se solidariza

me alegra nos alegra que se solidarice usted pero no vale con solidarizarse eso no vale eso no vale porque el gobierno ustedes el grupo que sustenta el gobierno se solidariza pero mientras tanto osakidetza a esta plataforma que ha estado encerrada en txagorritxu les ha echado a la calle no solamente eso

entonces menos solidaridad y un poquito más de dejar de palabras y pasar a los hechos y cuestione usted todo lo que quiera y vendremos a esta cámara las veces

necesarios estamos en nuestro derecho interpelaremos al consejero las veces que creamos necesarias y creo que ni usted ni nadie tiene licencia para cuestionarlo

un discurso de me solidarizo con el colectivo de pacientes

si la solidaridad es un discurso versus tratamiento farmacológico pues oiga los enfermos no quieren solidaridad quieren tratamiento médico quieren tratamiento farmacológico y quieren tratamiento curativo

no quieren un tratamiento que les permita que la enfermedad avance atacando cada vez más al hígado

de cirrosis o de cáncer entiende usted lo que quieren es como el resto de pacientes de cualquier otra enfermedad

me dice usted vienen ustedes aquí sin datos perdone esta parlamentaria

no lo sé no lo sé me contestó el consejero con que si este parlamento carece de datos es por la falta de transparencia

hace falta caradura sí señor para responder no lo sé cuando le bastaba llamar a cada hospital que no hay tantos en euskadi

responsable del servicio de patología o de digestivos sección

o sea no era tan difícil con una llamada telefónica se hacía y usted contestó que no tenía datos

en euskadi y eso está en la hemeroteca del parlamento y está en la página web así que como digo el discurso del consejero no está mal lo que está mal es lo que hace

y usted todos los pasos que se han dado setecientos cincuenta pacientes en un año si yo no digo

trabajado y que no hayan dado pasos el tema es aa cuántos pacientes afectan las decisiones en el año dos mil quince

lo que le vuelvo a decir su obligación es buscar financiación si no tiene presupuesto suficiente pida un incremento que este parlamento se lo dará

y si finalmente tampoco hace caso a proposiciones no de ley tendremos que venir con proposición de ley para que tenga que cumplir por obligación su obligación es tratar

y esa es la voluntad política de los grupos parlamentarios salvo el del pnv que por lo visto no quiere ni que sepamos cuál es el cronograma de trabajo que tiene previsto el departamento con los pacientes de hepatitis cien ni quiere que sepamos cuál es

vamos a tener para el año dos mil dieciséis eso es lo que dice esta

dígame usted qué pegas le ve a eso a solidarizarse con los pacientes de hepatitis cien a querer conocer los datos

de este gobierno díganos qué pegas tiene esta enmienda de transacción para que el pnv no la pueda aprobar

ustedes vienen a decir en esta tribuna cada vez que salen a responder a las preguntas que les formulamos o se debate sobre esta cuestión dice lo mismo entiendo que el discurso que usted nos ha traído hoy aquí pues obviamente es lo que ha dicho en consonancia con lo que tenía

consejero pero lo que no entendemos es lo que está pasando y no entendemos lo que está pasando porque vemos una falta de respuesta absoluta del gobierno vasco en relación a todas las incógnitas que hay en relación al tratamiento

con estos nuevos medicamentos y sobre todo porque como representantes políticos queremos respuestas y sobre todo porque queremos

tengan respuestas y no tienen respuestas porque los enfermos no entienden

que otras comunidades autónomas que en logroño que en madrid

se estén prescribiendo los tratamientos y aquí no se les están dando los tratamientos porque los enfermos no entienden que este gobierno

de enfermos que nos están llamando esos que son absolutamente prioritarios calificados como f cuatro

y los enfermos no entienden como decía que en logroño en madrid en sevilla se les están dando los tratamientos que aquí se les están negando y eso tiene un nombre eso es discriminar a los enfermos del país vasco

no tiene voluntad de hacer las cosas como las tendría que hacer y están encima está faltando a los compromisos adquiridos yo también voy a decirle desde luego

todo balones fuera todo excusas porque me parece muy bien que se priorice a los enfermos pero la priorización en absoluto puede servir de excusa para no dar la atención aquellos enfermos que los especialistas

y nos están diciendo los médicos y los especialistas que en muchos casos no se los pueden dar

y de acuerdo al diagnóstico y a la prescripción dada no se los pueden dar porque no tienen autorización ustedes me dirán qué es eso

desde luego no es seguir los criterios clínicos marcados por la estrategia esa estrategia del sistema nacional de salud abordada

aprobada por el nuevo ministro de sanidad el señor alfonso alonso

en la que ustedes no están cumpliendo y efectivamente no tenemos datos señor consejero usted sabrá por qué no quiere dar los datos porque

afectados hay en euskadi de hepatitis cien no tenemos datos señor consejero tenemos otra forma

pero lo que tiene que hacer usted es transparente asumir su responsabilidad

para conocer cómo está esta situación

menos echar balones fuera y sean ustedes resolutivos de una vez por todas reconozcan donde está el problema

que no es solo un problema económico o sea que en parte es un problema económico díganos por qué si es una

díganos si han gastado diez millónes este año y parece ser que veinte en total desde el dos mil catorce parece ser que no hay dinero díganos si realmente no hay dinero porque el señor aiartza aquí ha reconocido que no solo hay problema económico sino también organizativo díganos

para que si ustedes son incapaces de aportar la solución pues aportemos otros partidos la solución y la pongamos encima de la mesa eskerrik asko garrido andrea

señora garrido por empezar por el final escúcheme un poquito yo no he dicho yo he citado

garcía bengoechea le he citado con las comillas nos habla de incógnitas

en toda su argumentación en esta teatralización la suya toda esta teatralización suya se ha basado en una idea no hablo hoy también hoy también pero en otros momentos de todos estos actos se ha basado en una idea

resumirlo en la sobreactuada pregunta que dirigió al consejero en el pleno de control del veintiuno de mayo y le voy a citar a usted

pero añadiría un pequeño detalle ha hecho un papelón secundario euskadi está por delante

me parece muy bien que hable en su enmienda de criterios del plan estratégico quizás sería interesante que se lo leyese sí

y mire no me hable de la señora mato hábleme de lo que ha hecho el nuevo ministro de sanidad

y es la principal responsable por su incapacidad de todo este embrollo y de algún otro pero bien hablemos de lo que ha hecho su nuevo ministro ha hecho nada

de esto estoy seguro que volveremos a hablar y renegará de su ministro como aquel viernes renegó de su exministra

solidaridad sí solidaridad sí soy solidario

por otro lado rigor datos que usted no aporta ninguno no aporta ninguno no los tiene no los tiene no

no aporta nada no aporta nada en sus preguntas vacías parece mentira con su dilatada experiencia política

usted en ese pleno de control también en otra pregunta decía y le cito de forma escalonada pero qué es eso qué es eso bueno parece que ya lo ha entendido porque después de las

y de muchas más aportaciones incluso de representantes políticos de aquellas comunidades donde ustedes gobiernan

en su enmienda la señora blanco bueno aquí el único que ha dado datos he sido yo hasta el momento que yo haya visto hablaba anteriormente yo de rigor de que en osakidetza no se deja lugar a la improvisación de absoluta programación bueno usted me da la sensación de que tiene una estrategia

este rigor y esta falta de improvisación esta programación

un esquema de acción reacción acción de bildu y reacción del departamento de salud después de su acción

señora blanco que no que no siga por ahí que no se lo cree nadie que la ciudadanía ya conoce

tenía como único propósito propiciar y garantizar la máxima difusión del denominado informe foronda un informe que

sobre los contextos históricos del terrorismo en euskadi un informe que ustedes conocen

el gobierno se ha comprometido con el grupo socialista a poner en marcha lo que pedíamos en nuestra iniciativa que era dar a conocer este informe lo hará mediante la adquisición de ejemplares del informe foronda que acaba de publicar la editorial los libros catarata y también a través de

en el sistema educativo en bibliotecas en centros de documentación asociaciones de víctimas o medios de comunicación en consecuencia

enmendantes de nuestra iniciativa y entendiendo que se cumplen y garantizan los objetivos que perseguíamos

sí muchas gracias presidenta por su amabilidad presento

esta proposición no de ley efectivamente de la mano del grupo popular para pedir en este parlamento la creación de una comisión especial de investigación sobre el histórico trato de favor dado a los presos de eta por parte de la upv o mejor dicho por aclararlo por parte

de la upv las irregularidades e ilegalidades habidas y las responsabilidades evidentemente políticas que de esos hechos pudieran derivarse

el colectivo de víctimas del terrorismo que en los últimos tiempos está realizando un trabajo absolutamente descomunal y digno de aplauso

denuncia ante el tribunal supremo contra cinco militantes de eta recientemente excarcelados y que obtuvieron en su momento beneficios penitenciarios por la realización de

que estos etarras habrían obtenido sus títulos de forma irregular o fraudulenta por lo que se denuncia una supuesta falsedad documental y lo cierto es que aporta datos contundentes y en las próximas semanas y en los próximos meses

que en nuestra opinión demostrarían definitivamente que existió una trama dentro de la upv que tenía como objetivo fundamental beneficiar

de los que se dispone uno de estos etarras denunciados habría realizado el examen de acceso a la universidad diez años después de iniciar sus estudios universitarios otros dos habrían cursado sus estudios sin haber realizado el preceptivo examen de acceso a los estudios superiores

sin haber superado el examen de acceso para mayores de veinticinco años y en el último caso dentro de esa primera denuncia en su expediente aparecería con dni falso y una fecha de acceso para mayores de veinticinco años también falseada

habría decenas de casos semejantes a estos en aquella demanda de covite se pide que se impongan las condenas que correspondan por el delito de falsedad documental además de que se anulen todos aquellos títulos obtenidos o los estudios universitarios supuestamente de manera fraudulenta covite amplió ayer mismo la denuncia inicial en este caso ante la audiencia nacional y en este caso contra otros seis etarras los datos son evidentes y evidencian la existencia de una trama mantenida

durante largos años dentro de la upv hay ya digo casos como los que he citado antes y en esta nueva denuncia se aportan nuevos casos como por ejemplo el caso de inés del río que inició periodismo

en fin no hizo el examen de selectividad ni la prueba de acceso destinada a mayores de veinticinco años imprescindibles además pese a estar en prisión se matriculó en grupos reservados a alumnos que toman clases presenciales o el caso de ignacio

con el dni también falso y la fecha de nacimiento que aparece en su registro es también falsa y se inscribió en el grupo veintiséis cuyo horario era de tarde y presencial

magisterio en mil novecientos ochenta y ocho y se matriculó con dni número treinta y tres millónes trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres y según su expediente

el uno de enero de dos mil once domingo y veinte años después de iniciar sus estudios universitarios o el caso de txikierdi número de dni que aparece en todos sus documentos de su expediente

también falso o el caso de elías fernández

no consta tampoco prueba de acceso tampoco en el caso de inmaculada noble que se matriculó en magisterio en la modalidad de clase presencial son innumerables

concretos que demuestran que este asunto tiene que ser investigado a fondo políticamente y por lo tanto por este parlamentario hay muchos datos ya concretos que conocemos y que se van a conocer en las próximas semanas que evidencian lo que yo decía antes la existencia

de una estrategia diseñada por la propia

supuestamente para desde dentro de la upv favorecer

pudieran no solamente beneficiarse de beneficios penitenciarios de manera fraudulenta sino utilizar unos títulos que realmente no les corresponde más allá de lo que determine la justicia en torno a estas denuncias de covite a la vista del trato de favor recibido por los presos de eta por parte de determinados elementos de la upv interesa en nuestra opinión poner en marcha una comisión especial de investigación en esta cámara

dicho trato depurar las responsabilidades que correspondan y en última instancia conocer la verdad

asesinatos atentados y amenazas este puede ser un buen momento para dar los pasos necesarios que lleven

universitario y a través de las investigaciones políticas que seamos capaces de llevar a cabo esclarecer esta historia en los últimos tiempos se habla del relato de la necesidad de construir el relato de la necesidad de contar todo lo que ha ocurrido en euskadi en las últimas décadas evidentemente pensamos que esto también debe salir a la luz debe ser investigado para conocer las responsabilidades de todo tipo que pudieran

en esta tremenda historia no olvidemos que consecuencia del trato de favor

muchos de ellos habrían obtenido beneficios penitenciarios gracias a los cuales habrían sido excarcelados y recientemente por cierto y otros podrían serlo en el futuro no olvidemos la obtención de cursos y títulos universitarios de manera fraudulenta no olvidemos que a la vista de los hechos gravísimos ante

los ciudadanos necesitan necesitamos conocer la verdad de los hechos ocurridos y a los representantes públicos determinar todas las responsabilidades políticas que correspondan esta iniciativa no ataca a la upv es justo lo contrario pretende repasar la historia conocer la verdad y hacer justicia saber qué pasó

por lo tanto no por la upv sino por elementos de dentro de la upv una estrategia perfectamente diseñada para favorecer a los presos de eta que duró

la obtención fraudulenta de determinados títulos y el acceso a beneficios penitenciarios así lo atestiguan

de distintos profesores algunos de los cuales han mostrado su disposición de comparecer en este parlamento así lo atestiguan informes policiales no podemos ni queremos admitir que quienes participaron de esta trama

o sigan sin más en sus puestos de trabajo mientras decenas de profesores universitarios que vivieron amenazados o tuvieron que exiliarse vivan

como merecían y siguen mereciendo en fin esta es la propuesta que planteamos que planteo de la mano del grupo popular a quien evidentemente

su firma y su colaboración para defender conjuntamente esta iniciativa justa y necesaria gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta efectivamente como se ha dicho ya por parte del representante de upyd

eco de unos hechos que denunciaba el colectivo de víctimas

covite y que provocaron efectivamente y siguen provocando preocupación escándalo también puesto que se trataba efectivamente de una supuesta comisión de delitos

o como desde luego a nuestro juicio supone en todo caso actuaciones irregulares que afectan

su propio crédito y que al parecer tenía por objeto beneficiar a presos etarras por lo que efectivamente ayer en comisión parlamentaria

directamente al rector de la universidad en la denuncia referida se señala a un grupo de terroristas concreto no voy a repetir se dan con nombres y apellidos se hace referencia a sus expedientes académicos personales y donde consta efectivamente pues que

a la universidad que lo hicieron muchos años después sin ningún tipo de control

a que realizaron los estudios universitarios en la upv sin tener ningún derecho a hacerlo es imprescindible por tanto saber qué pasó qué pasó durante todos esos años en la upv para que esto pudiese ser así todos los casos que se nos han

nos llenan de estupor y desde luego no es la primera vez que esto pone en cuestión el sistema de control

digamos falló alrededor de los estudios de los presos etarras en la upv en todos estos casos afecta a presos

se favoreció el curso de sus estudios la obtención de títulos porque con ellos efectivamente obtenían beneficios penitenciarios redención de penas

que en muchos casos han permitido su excarcelación ayer le preguntábamos

le preguntábamos cómo es posible que se pudiesen matricular en la upv

y se comprobaran las preceptivas pruebas de acceso cómo es posible que pasara esto en tantos casos porque esto puede ser

falla un control en un momento dado pero cómo es posible que en tantos casos afectando a tantas personas

sin garantías sin ningún tipo de control sin pruebas de acceso ni selectivad ni la prueba de mayores de veinticinco años sin que se comprueben

pasan cuando todo esto es obligatorio para realizar estudios en la upv

quiénes son los responsables de todo esto porque aquí nadie está acusando a la upv

elementos profesores de la upv personal desde dentro de la upv miraba para otro lado aquí fallaron los controles alguien tiene que

no menoscaba el crédito quien presenta la denuncia sino quien efectivamente realiza actuaciones de manera irregular

de la propia universidad pública independientemente o más allá de lo que diga la fiscalía

y de lo que determine la justicia le planteábamos al rector creemos que es preciso una explicación un análisis por eso creemos que es necesario abrir un proceso de análisis sobre lo que ha pasado en la upv durante todos estos años

una vía de investigación que por lo menos desde el ámbito político nos dé claves claves verosímiles

efectivamente acotar las responsabilidades de todo aquello recientemente hemos conocido además y

acaba de aprobar un plan de oferta de titulaciones a presos que cumplen sus penas fuera del territorio español

desatendiendo los informes negativos de las facultades que no consideran posible responder

y que no disponen según los responsables de las facultades de elementos de control mínimos que efectivamente posibiliten que den verosimilitud a esas garantías creemos

la tentación los presos de buscar otro subterfugio para tratar de a través de ese instrumento buscar

nosotros pensamos que esta sociedad necesita saber la verdad y cuando se habla de memoria y en esta cámara lo hacemos mucho últimamente cuando se habla de memoria también tendremos

y cómo se actuaba en cada uno de los ámbitos institucionales en relación con los presos de eta

qué pasó quién estuvo tratando de privilegiar en determinadas instancias a los presos de eta

quién lo permitió necesitamos saber y yo creo que es bueno que se sepan esas cosas qué pasó en la universidad durante tantos años nadie debe interpretar esto desde luego como un ataque al revés

salvaguardar también el crédito de la upv y para ello creemos que es necesario saber conocer la verdad y lo que las víctimas del terrorismo quieren que se aclare es si los beneficios penitenciarios

si responden a criterios de legalidad o no si se han obtenido conforme a la normativa a la legalidad

o no o se han falseado y si realmente les corresponde esos beneficios o no eso es lo que se quiere saber y me quiero referir para no repetir argumentos a seguramente

se aportaron los expedientes no hubo ninguna condena estuvo en juicio y no hubo condena luego

que eso no es así en relación respecto al juicio es muy importante saber que lo que se denuncia hoy no es lo que se denunció entonces

se denuncia efectivamente la presunta comisión de un delito de falsedad documental por uso o presentación a sabiendas de su falsedad de esos documentos

era en aquel caso una denuncia por prevaricación a determinados profesores de la upv y en ese juicio efectivamente se les absuelve del delito de prevaricación

el umbral de la gravedad y porque según aquella sentencia el control lo debió de imponer la upv y no el profesor o sea se les absuelve

sino porque se les absuelve a los profesores de responsabilidad porque entiende que la responsabilidad recaía en la upv no en el profesor porque la libertad en aras en la libertad de cátedra

a los presos en función de lo que considerasen oportuno a mí me parece que esto es muy importante que se sepa y además me parece también sustantivo que el párrafo leer un párrafo

contesta al supremo cuando se le manda la denuncia de covite y efectivamente

los presos pertenecientes a la organización terrorista eta esto lo dice la fiscalía de bizkaia

extrañas circunstancias que aporta falta de datos incluso al inicio de los propios expedientes puesto que no constaba la vía de acceso en muchos de ellos

y en esta es la cuestión fundamental ni tales circunstancias ni siquiera las que finalmente fueron objeto de la acusación en el juicio anterior ampliar el sistema los efectos de quienes estaban en centros penitenciarios fueron consideradas constitutivas de delito solo inadecuación a la legalidad vigente y en definitiva un incumplimiento de los requisitos exigibles por el sistema luego los demás los que se han prestado a hacer la selectividad para poder optar a la upv

pues deben ser idiotas porque efectivamente saltándose sin hacer la selectividad o sin hacer la prueba de los veinticinco años pues puedes entrar

y hay que poner en cuestión algún tipo de titulación en relación con esto pues al parecer no

yo creo que es muy importante que sepa porque el rector decía no

y eso no es cierto aquello no se juzgo lo que se dijo en esa sentencia es que no entraban a estudiar el fondo del asunto y esto es muy importante que en el parlamento se conozca

estos notables y sobresalientes que se conseguían sin examinarse simplemente se matriculaban de catorce asignaturas solo hacían un examen luego lo demás eran trabajos que no se sabía quien los realizaba sin ningún tipo de control llegaban en sobres

solventado no se entró al fondo del asunto simplemente se planteó yo creo que ahora que estoy diciendo que no se va contra ese delito de falsificación de expedientes

los casos concretos en los que no se cumplían los requisitos de acceso es decir yo creo que es importante decir y explicar lo que decía el juez

dijo en relación con el sistema con los estudios de presos en la universidad es esto ha quedado demostrado que es un reino de taifas todo ello merece un reproche

ético de aquellos responsables que debieron armonizar el derecho a la educación de los internos con un control que asegura que asegurara que la enseñanza se imparte en las condiciones

en ese juicio se aporto en concreto el caso de kubati como decía antes catorce asignaturas solo hizo examen de una todo lo demás trabajos ad hoc así se saca títulos universitarios cualquiera es verdad que es preciso releerse las sentencias porque cuando tenemos que entrar en el fondo de la cuestión a unos profesores no les condena por prevaricación pero en todas las sentencias

ha quedado demostrado y constatado que hay enormes irregularidades en una buena parte de los expedientes de los presos etarras

hoy se está analizando y trajimos al parlamento una denuncia concreta en relación

con los expedientes de acceso a la universidad con el incumplimiento de las pruebas de acceso y la universidad pretende seguir mirando al otro lado y todos los grupos de esta cámara ayer a excepción de upyd y del grupo popular

un escándalo que se nos ocurriera preguntarle al rector por estas cosas

un ataque a la universidad se nos decía desde bildu ayer que les hemos visto insultar a todas las instituciones magistraturas del estado durante todos estos años insultar cuando menos al presidente de gobierno a los ministros a esta propia cámara

tratando de menos cavar el crédito de todas las instituciones y resulta que ayer se llevaban las manos a la cabeza porque nosotros simplemente le preguntáramos al rector exactamente si

covite para conocer exactamente los términos de la denuncia si se había puesto

para conocer efectivamente si la denuncia de covite responde a la realidad y se esos expedientes de estos presos concretos

olvidémonos de las elucubraciones vayamos a los casos concretos es muy fácil

en relación con informes de la policía de la guardia civil que habla efectivamente de tramas y estrategias perfectamente organizadas y diseñadas pero

no no vayamos a los casos concretos oiga en la upv los presos a diferencia del resto de los alumnos

sin tener la selectividad o las pruebas de acceso eso es lo que tenemos que saber oiga y la upv

independientemente de las sentencias de que la justicia actúe independientemente de que eso tenga o no consecuencias en relación a la redención de penas o a la excarcelación de presos

amaitzen joan oyarzabal jauna oiga si se descubre que efectivamente

esos estudios universitarios no los pudieron realizar independientemente de que los hicieron de manera en situaciones extrañas como dice aquel juez oiga la upv va a hacer algo

y la upv va a seguir refrendando esas situaciones eso es lo que tenemos que saber yo creo que es muy importante y termino ya que esta cámara de una vez por todas y después de veinte años en las cada dos por tres salen casos

esto los jueces no no y qué pasa que entonces no cabría no tendría ningún sentido ninguna comisión de investigación aquí

no hay un reproche político como dicen los jueces un reproche ético que hacer eskerrik asko oyarzabal jauna

egunon guztioi señorías el grupo socialista respalda

con todas las garantías subrayo con todas las garantías a la población reclusa en las condiciones establecidas por la legislación vigente como vía muy importante para la reinserción

y no este parlamento los competentes para en su caso investigar los supuestos situaciones de falsificación casos de falsificación que denuncia covite o eventualmente cualquier otro colectivo o persona individual señorías lo que nos trae aquí los dos grupos

el grupo popular perdón afirmalo siguiente el parlamento vasco acuerda crear una comisión especial de investigación

por parte de la universidad del país vasco las irregularidades e ilegalidades habidas y las responsabilidades que de esos hechos pudieran derivarse

presunto trato de favor afirma trato de favor por parte de la universidad

irregularidades e ilegalidades habidas oiga señorías esto es un ilícito penal y como ilícito penal

responsabilidad o sanción penal hasta ahora señorías no ha habido ningún ilícito penal ninguna cosa juzgada que haya dado lugar a ilegalidad alguna irregularidades ilegalidades no señorías el delito de falsificación de un acta

es un delito grave es un delito con consecuencia penal y la responsabilidad penal es individual y son los jueces

hasta la fecha los competentes para investigar el delito juzgarlo

lo juzgado por eso el colectivo de víctimas del terrorismo hace lo que tiene que hacer

su convicción de que ha mediado falsificación en algunos casos denunciarla ante los tribunales

señor oyarzabal señor maneiro una comisión de investigación parlamentaria de la que no puede derivarse ninguna responsabilidad política

ni responsabilidad académica porque la universidad es autónoma señoría si se acuerda ni responsabilidad penal

señorías no puede ser el procedimiento adecuado y es del procedimiento entiendo de lo que hablamos porque no hablaremos de las víctimas no hablaremos de las víctimas porque todas las víctimas del terrorismo saben que los socialistas

que su sufrimiento ha sido el nuestro durante muchos años y sigue siendo y que el respeto a la justicia a la dignidad y a la memoria es siempre la guía de nuestra acción política para ir cerrando las heridas que el terrorismo ha ido dejando en nuestra sociedad

la responsabilidad política nos ha obligado obliga a que el parlamento actúe en paralelo incluso en paralelo a la justicia para el esclarecimiento de determinadas actuaciones que puedan parecer irregulares o delictivas

responsabilidades políticas y así ha sucedido en esta cámara con múltiples comisiones de investigación sobre cosas que estaban siendo efectivamente en paralelo investigadas por los tribunales

en sí mismo en su expresión un delito constatado en la expresión

riza el rizo señorías porque se nos pide investigar no al mismo tiempo que la justicia lo está haciendo sino cuando la justicia ya ha emitido su sentencia absolutoria eso es lo que se nos pide investigar más aún cuando la justicia ha dicho que esa era la cosa juzgada

es decir tiene la verdad judicial de su lado cosa juzgada o

y oiga los que creemos en la constitución los que defendemos la constitución sabemos que la prescripción es una institución jurídica contenida en el artículo nueve punto dos de la constitución que precisamente lo que afirma

por el paso del tiempo las situaciones sencillamente decaen no todos los delitos decaen pero estos sí y ese fue el razonamiento que utilizó precisamente ayer lo supimos no sabemos cuándo la fiscalía

al afirmar que lo que se estaba tratando de plantear ante la fiscalía de bizkaia por parte de covite o era cosa juzgada

por eso señorías cosa juzgada o cosa prescrita por eso resulta inadmisible

se beneficie o pueda beneficiarse de una reducción de su pena con unos estudios para los que falsificó documentos en un pasado lejano puede resultar o resulta inadmisible que pudiera beneficiarse

que deben corregir las instancias judiciales que velan por el cumplimiento efectivo de las penas impuestas no es una tarea que corresponda a este parlamento y desde luego es del todo inaceptable señorías que estos supuestos

una mancha de sospechas sobre la universidad del país vasco y quiero recordarles lo siguiente porque ayer también se especulaba al respecto fue en el año mil novecientos ochenta y tres

cuando se firmó un convenio entre la secretaría de estado de universidades e investigación la dirección general de instituciones penitenciarias

para abrir la posibilidad siendo felipe gonzález presidente para abrir la posibilidad

es en mil novecientos ochenta y ocho cuando siendo rector emilio barberá se convenia con la uned de bergara siendo don iñaki maiza el rector

se convenia con la upv para empezar a ofertar estudios universitarios a la población reclusa situación que sigue hasta el año dos mil tres en el que siendo jose maría aznar

se modifica la ley orgánica general penitenciaria para emitir el requisito de conveniar

de dos mil tres a dos mil quince sigue hasta la fecha en dos mil cuatro sin embargo se elabora un protocolo por parte de la universidad un protocolo que solo ha sido aplicado a la población

españolas por tanto señorías durante todo este tiempo

ha habido diligencias presentadas ante

se presentó una querella ante la audiencia nacional por parte de la avt que fue archivada

se archivaron otras diligencias además presentadas ante la audiencia provincial de gipuzkoa archivada y ante el juzgado de instrucción número tres

se presentaron unas diligencias que son de las que hablábamos ayer unas diligencias un procedimiento judicial en la que se han examinado más de quinientos

académicos en las que han sido imputadas ayer nos lo recordaban treinta y seis personas y en las que han declarado no solamente el personal docente sino el personal de administración y servicio los rectores de la época que se examinaba

y ha dado lugar a una sentencia absolutoria que significa eso que todo el mundo es inocente

ustedes saben muy bien y yo ayer también se lo recordaba que en la verdad judicial puede que alguien sea declarado inocente haya resultado culpable

entre las democracias asentadas constitucionalmente y los países totalitarios y las sociedades totalitarias

que un culpable esté en la calle o un inocente en la cárcel y miren señorías francamente

ustedes sencillamente aquí presentan una situación de facto y pretenden

no sabemos a quién no sabemos a qué no sabemos en qué tiempo no sabemos quienes van a acudir con qué competencias y si los que no acuden

y culpables a los que no acuden oiga qué responsabilidades podrían devenirse de semejante investigación sería un arreglo justo

quienes van a venir con qué procedimientos con qué fuentes qué tipo de responsabilidades a derivar de todo esto señorías esto no da lugar desde luego es un procedimiento completamente equivocado completamente incoherente

una sentencia absolutoria sobre el periodo que ha concluido tiene también una prescripción y por lo tanto estamos a aquellos nuevos asuntos que puedan surgir que por cierto se planteaban ayer ante la audiencia nacional son los tribunales repito los competentes para poder llegar a atender a entrar a conocer sobre estos ilícitos

estrategia organizada mantenida en el tiempo por parte de la universidad del país vasco para facilitar los estudios universitarios a los miembros de eta presos

es verdad es verdad que ha habido denuncias anteriores a esta última por documentos académicos falsos la de noviembre del dos mil trece y la fiscalía de bizkaia ha decidido archivar las diligencias de investigación una vez más

el querer dejar a covite fuera de este debate con todos los respetos puesto que nos encontramos ante un nuevo intento de desprestigiar y destruir el entramado institucional vasco

se le ha sumado el señor oyarzabal mediante qué mediante falsas acusaciones basadas en denuncias que hasta ahora solo han dado lugar a sentencias absolutorias o que se archivan en fases de instrucción acusaciones fundamentadas en noticias que recogen ciertos medios de comunicación

es por ello que no apoyamos la creación de una comisión especial de investigación la universidad del país vasco ha colaborado con las instituciones judiciales siempre que se le ha requerido y así lo seguirá haciendo tal y como explicó el rector ayer en sede parlamentaria vuelvo a repetir que han sido quinientos los expedientes requeridos para investigar los últimos años

tampoco podemos olvidar que el tribunal constitucional ha avalado la implementación del protocolo para la atención a personas internas en centros penitenciarios

un protocolo que compete elaborar a la propia universidad junto con otras muchas actividades competencias que tanto el gobierno vasco como este parlamento siempre han respetado

en el que respaldamos la oferta de estudios universitarios con todas las garantías a la población reclusa en las condiciones establecidas legalmente correspondiendo a los tribunales como bien ha explicado la señora celaá en su caso entrar a conocer los supuestos de falsificación de denuncia presentados por covite así mismo reconocemos el esfuerzo de la upv ehu el esfuerzo que realiza para garantizar la calidad y seguridad de toda su oferta

avalado por el tribunal constitucional como he comentado un instrumento que en base al ejercicio de la autonomía universitaria regula las condiciones en las que ha de impartirse la docencia a distancia

en la comisión comprobamos que el grupo nacionalistas vascos eh bildu y el grupo socialista no quieren investigar qué es lo que durante décadas ha ocurrido en la upv no quieren investigar políticamente lo que ha ocurrido en la upv queda claro por lo tanto que ellos

conozca la verdad esto es hombre es lógico que el señor isasi defienda la obtención de títulos universitarios

es lógico que usted defienda a los presos de eta pero ciertamente llama la atención que

insistan en la idea de que no es necesario investigar absolutamente nada e insistan en la falsedad

es ensuciar el nombre de la upv una falsedad que no vamos a admitir en fin se nos ha incluso atacado o acusado de pretender

el entramado institucional vasco y se nos ha acusado de ensuciar el nombre de la upv no queremos que se conozca la verdad y ustedes no quieren conocer la verdad o mejor dicho

perfectamente cuál es la realidad lo que pretende es taparla para que la ciudadanía no hable de esto

ustedes lo que hacen es ensuciar el buen nombre de covite que ha planteado dos denuncias con datos muy concretos que evidencian que efectivamente se han cometido irregularidades y por cierto ni la denuncia

ante el tribunal supremo ni la denuncia de ayer mismo ante la audiencia nacional han sido archivadas

por lo tanto dejen ustedes de falsear la realidad y otra cosa no tiene nada que ver lo que ocurra en el ámbito de la justicia con lo que podamos hacer en esta cámara

respeten por lo tanto el ámbito parlamentario respeten y digan la verdad en relación a las sentencias que ha habido en relación a estas cuestiones porque no ha habido sentencias absolutorias y si quieren conocer la verdad infórmense antes pero no ha habido sentencias absolutorias el señor iñaki oyarzabal también

qué es lo que decía aquella sentencia de aquel juzgado en bilbao

de dicho delito por considerar que no alcanzaba el umbral de gravedad porque el control lo debió de imponer la upv y no el profesor

de cátedra pero esto no implica en absoluto que no podamos investigar todas esas irregularidades que existieron y que están perfectamente documentadas

porque hay efectivamente muchas la jueza en aquel caso tal como decía el señor oyarzabal hablaba de un reino de taifas todo ello merece un reproche ético de aquellos responsables que debieron armonizar el derecho a la educación de los internos con un control que asegurara que la enseñanza

está perfectamente acreditado que hubo irregularidades e ilegalidades de todo tipo está perfectamente demostrado

hablan de memoria hablan de memoria histórica hablan de relato bien

por qué porque queremos saber la verdad y porque las consecuencias de todo aquello siguen estando presentes a día de hoy como consecuencia de todo aquello se han obtenido beneficios penitenciarios y se han producido excarcelaciones hasta

y porque no queremos que los presos de eta disfruten de una serie de títulos universitarios que no les corresponde por todo esto tiene que ser absolutamente investigado y el asunto está ya en manos del propio ministerio de educación que

de la asociación de víctimas del terrorismo que decía lo siguiente dado que por lo expuesto en el presente escrito de petición y el informe que acompaña

en la concesión de estudios y títulos universitarios por la upv a presos de eta le pedimos que se inste al ministerio de educación y ciencia

investigarlo desde luego nosotros pensamos que es una trama evidente orquestada y mantenida en el tiempo con el objetivo de beneficiar

hablen con profesores universitarios pregunten infórmense hablen con covite observen las denuncias vean los datos no insulten a la inteligencia no digan que venimos aquí a desprestigiar a la upv todo lo contrario

de no querer saber la verdad y no acusamos a la upv acusamos y décimos que determinados elementos desde dentro de la upv defendieron y

en defensa del conjunto de la sociedad también
nosotros en definitiva queremos conocer la verdad ustedes quieren taparla eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta y muy brevemente porque efectivamente yo creo que los argumentos están

es preciso por lo menos rebatir algunas cosas y desde luego nos venía a decir aquí el señor isasi

porque nunca condenaron los atentados contra la upv sí los atentados los ataques a la upv los ataques terroristas los ataques a profesores las amenazas

siempre han defendido a la upv a qué upv a la upv que sufría atentados

cuándo apoyaron ustedes a la upv yo creo que no tiene legitimidad para venir aquí y hacer el discurso que hace

creo que no ataca a nadie y eso lo hemos escuchado de todos los grupos en otras ocasiones nosotros hoy creo que tenemos legitimidad para pedir simplemente este análisis razonable porque efectivamente como se ha dicho las sentencias no absolvieron a nadie de las cosas que se han dicho aquí

se ha rebatido se ha aportado algún tipo de documentación que diga esto que dicen los de covite no es verdad el expediente de estos terroristas

no responde a la verdad porque hicieron la selectividad tal día

no no se ha rebatido y llevamos muchos años y no se ha rebatido ni se han aportado pruebas en los juicios que rebatan que los expedientes contienen irregularidades falsedades

esos expedientes y esas titulaciones entonces por qué se quiere acusar al que denuncia

los expedientes de estos cinco presos a los que alude covite están en regla

no lo hace no hay pruebas no se rebaten ninguna de las acusaciones porque efectivamente esos expedientes los expedientes que obran en poder de la universidad corroboran de que muchos de esos presos accedieron a los estudios universitarios

mediante un procedimiento irregular falseando los datos falseando los exámenes

no ya si hubo trato de favor o no pero a mí sí que me gustaría saber y creo que a muchas ciudadanos también si durante un tiempo hubo profesores que se escudaron en su libertad de cátedra para beneficiar a los terroristas

mientras la banda terrorista eta amenazaba a una parte de la población y también a la universidad y a muchos profesores que se tuvieron que marchar me gustaría saber y yo creo que a muchos ciudadanos les gustaría saber también

eta amenazaba a algunos de sus compañeros y los expulsaba de la universidad había profesores que escudándose en su libertad de cátedra beneficiaban a los presos de eta beneficiaban

yo creo que independientemente de si eso va a ser condenado o no por prevaricación

oiga no queremos saber en aras a la memoria de

va a parecer que ustedes eran los salvadores de la universidad ustedes hacer memoria creo que le viene bien a esta sociedad para saber exactamente qué estaban haciendo ustedes qué estaban haciendo los profesores que seguían sus propias estrategias

políticamente sano y desde luego no habrá memoria ni se podrá mirar al futuro

si lo que ustedes hacen simplemente es tratar de esconder lo que pasó

que esta cámara pueda investigar y empeñarse todos con el acompañamiento triste de los socialistas en este caso por que yo esto no lo hago porque

sabe por qué lo hago señora celaá porque yo llegué hace muchos años a esta cámara

en relación a las titulaciones de los presos profesores que estaban ligados al partido socialista

miembros de sindicatos próximos al partido socialista no fue covite fueron esos profesores los que nos alertaron de lo que estaba pasando y creo que por dignidad de todas aquellas personas que sufrieron

ustedes tendrían que estar en este lado defendiendo que se esclarezca la verdad no para condenar a nadie no me hable usted de cárcel aquí no se trata de meter en la cárcel a nadie

y para poner a todo el mundo en su sitio y para que no vengan aquí de salvadores los que estuvieron provocando el sufrimiento de este país durante tantos años y afectando además al crédito desde luego
de la universidad pública que se sufraga con los fondos de todos nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak

aquí la dignidad política del grupo socialista es la que yo represento y yo he perdido compañeros de escaño que se han dedicado a la educación

como fernando buesa yo he perdido y he perdido muchos compañeros en el camino y he sufrido violencia de persecución durante muchos años más años que usted señor maneiro por lo tanto sabemos muy bien los socialistas de que estamos hablando y sabemos cómo recuperar la dignidad de la universidad pública vasca

o es que resulta que aquí o afirmas la comisión de investigación sí o sí para conocer qué verdad su verdad su verdad señor maneiro

la suya señor oyarzabal su verdad su verdad la que le contaron hace muchos años

juzgada porque ustedes dicen que no hay sentencia absolutoria y es mentira la sentencia concluye como sigue la actuación desarrollada por los acusados no integra
por no concurrir ni elemento objetivo ni el subjetivo mesedez isiltasuna el delito entero de enjuiciamiento

más que concluir con el dictado de una sentencia absolutoria

mesedez zuen txanda izan da isiltasuna modulen por favor y tenga el respeto porque señor maneiro yo no le voy a

no le voy a tolerar sin protesta obviamente estamos en la democracia

les miraba a ese grupo menos mal menos mal que le miraba verdad

hemos ensuciado el nombre de una asociación de víctimas del terrorismo

por tanto qué ocurre señor maneiro que aquí o se monta la comisión de investigación que dice el señor maneiro y el señor oyarzabal o no queremos conocer la verdad pero qué verdad qué verdad cuál cuál qué verdad oiga

a la comisión qué garantías con qué garantías qué investigamos a qué personas en qué tiempo con qué fuentes quiénes van a venir a contárnoslo usted decía ayer que vendrían a contárnoslo aquellos que por miedo se marcharon y no denunciaron

pero no obstante algunos de los que se quedaron

y esto que les acabo de leer es su conclusión no me extraña no me extraña que la fiscal de la audiencia de bizkaia diga oiga mire usted están prescritos

o bien ya fueron juzgados y no se aprecia delito por lo que no cabe isiltasuna

isiltasuna mesedez mesedez salvo la verdad
la revelada la de los diez mandamientos la verdad judicial es lo más aproximado que podemos estar a la realidad y desde luego yo que soy favorable a las comisiones de investigación

ningún resultado porque no se pueden derivar ni consecuencias políticas

ni consecuencias penales porque nosotros no somos quienes para sancionar por lo tanto todo lo demás sería un arreglo injusto absolutamente injusto

favor de opiniones subjetivas de la verdad subjetiva de esa verdad entre comillas que desde luego no reúne las condiciones

por todo ello con toda la dignidad de los que nos antecedieron conociendo que ha podido haber irregularidades que las hubo en algún tiempo porque se trató como presencial lo que no era presencial con todo ello

por eso no les vamos a acompañar con todo respeto

que lo hemos sufrido y con todo respeto a lo que significa nuestras instituciones públicas universidad

eskerrik asko pues nuestro grupo tampoco admite

usted diga que queremos ocultar la verdad y que nosotros queremos ensuciar el buen nombre de la universidad del país vasco nosotros únicamente décimos que corresponde a los tribunales

entrar a conocer los supuestos ilícitos si los hubiera juzgarlos y sentenciarlos y asumir las sentencias y nosotros lo hacemos

y en ese caso reitero lo que el rector de la universidad del país vasco dijo ayer que la universidad había colaborado con las instituciones judiciales siempre que se le había requerido y que lo iba a seguir haciendo

es que diga nuevamente aquí que todo esto se lleva a cabo por una trama una estrategia organizada mantenida en el tiempo por parte de la universidad eso no lo podemos admitir

es efectivamente eso mediante estas palabras es difamar y ensuciar el buen nombre de la universidad del país vasco y no lo vamos a admitir